en que no es lo mismo predicar que eso hace usted muy bien que dar trigo que en este caso es difícil kontsumobide lleva un año trabajando

nadie discutirá que la directora actual de kontsumobide al igual que la anterior y las personas que trabajan en kontsumobide

muy importante y que el proceso de mediación y la absolución a buscar para las personas afectadas por las aportaciones financieras subordinadas

y de fagor pues no es un tema sencillo

y no tenga usted duda de que hemos intentado buscar la mejor solución desde que kontsumobide hizo público

los servicios de kontsumobide han prestado atención diariamente a todas y cada una de las personas que se han acercado a solicitar información al respecto el personal del instituto ha informado sobre la situación y por descontado

que la labor que kontsumobide ha realizado en este proceso es la de mediación

el veintitrés de septiembre ante la comisión de salud y consumo de este parlamento en la que no pudimos disfrutar de su presencia pese a la preocupación que usted tiene por el tema ya sé que luego en la réplica me va a decir usted que es un parlamentario solo pero yo tampoco tengo dos consejeros de salud

explicó claramente lo que significa la mediación dada la confusión que al parecer existía entre los conceptos de mediación

me va a permitir recordar lo que dijo la mediación es una técnica de resolución alternativa de conflictos

el mediador ayuda para que los participantes en forma cooperativa puedan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable el mediador no es un árbitro pues no tiene el poder de imponer un resultado a las partes en conflicto no tiene poder para tomar decisiones y los participantes pueden o no llegar a un acuerdo

mediador lo que ha hecho ha sido posibilitar que las partes se sienten y puedo asegurarle que conseguir que la entidad emisora

y las comercializadoras todas ellas se sentaran voluntariamente para tratar de llegar a un acuerdo no ha sido tarea fácil

bere egitekoa a nadie se le escapa que las resistencias iniciales no presagiaban que se pudiera llegar siquiera a acuerdo

alguna acuerdo que solo se podía alcanzar si las partes voluntariamente se ponían de acuerdo por mucha proposición no de ley que votáramos tenían que ponerse de acuerdo las partes y la comisión nacional del mercado de valores además tenía que aceptar el acuerdo

en ocasiones se ha salido del guión tratando de forzar la balanza todo lo posible hacia las personas consumidoras atendiendo a su verdadero objeto de atención las personas consumidoras a pesar de ello como mediador kontsumobide ha realizado su trabajo

para presentar una nueva alternativa estamos hablando del canje que eroski propuso realizar a las personas titulares de sus aportaciones

su futura reestructuración financiera sustituyendo el bono a perpetuidad por otro bono por valor del cincuenta y cinco por ciento

ofrecerá unos intereses de euribor más tres por ciento

de un quince por ciento de su valor inicial negoziazioaren emaitzen alderdi batzuk ez dituzte argi zabaldu komunikabideetan

uxatzeko el aspecto al que nos referimos es el siguiente los intereses cobrados hasta la fecha como conocen no deberán ser devueltos ni tan siquiera actualizados

haber adquirido renta fija en cuanto a las acciones judiciales que usted me ha señalado desde el inicio de este conflicto han sido diversas las personas

de asociaciones de personas consumidoras se han dirigido a los tribunales un juez como es obvio puede imponer una solución concreta la que entienda más justa un mediador kontsumobide en ningún caso ha desechado la vía judicial sino que muy al contrario siempre ha señalado a todas las personas que han buscado información

para quien quisiera recurrir a ella en estos momentos a pesar del canje voluntario la vía judicial sigue abierta sobra decir que quién no esté conforme con la propuesta planteada

de dirigirse a los tribunales e interponer una demanda individual o colectiva desde kontsumobide a las personas que han solicitado información respecto a la vida judicial les hemos facilitado la información

así como también la referencia de las asociaciones de personas consumidoras

y acompañarles en el proceso judicial lo que entiendo que no podrá pretender usted es que kontsumobide asuma el liderazgo de interponer las demandas judiciales porque no es su función guztiok dakigu hau ez dela erakundearen lana

gezur biribila litzateke y creo que es fácil de entender

no va a personarse ni a interponer las demandas

que a pesar de ese punto cuatro al que usted me hacía referencia en la interpelación la enmienda transaccional aprobada contenía también un punto tres cuya responsabilidad y competencia no dependía de este gobierno y decía el parlamento vasco

a que adopten las medidas necesarias para que se proceda a rembolsar de forma inmediata el cien por ciento del capital invertido a aquellos afectados con un perfil de riesgo conservador que así lo deseen y a todos aquellos consumidores a quienes se les trasladó una información insuficiente tendenciosa incompleta o engañosa a tal fin se requiere a las empresas emisoras y entidades bancarias comercializadoras a que se reúnan con los afectados para encontrar una vía de solución a pesar de no ser competencia de este gobierno en la labor de mediación y tratando de acercar posturas este punto también ha sido puesto sobre la mesa instando a las entidades emisoras y comercializadoras

y cumplieran con el contenido de la misma obviamente ni kontsumobide como mediadora ni el gobierno pueden obligar el cumplimiento de la misma se lo decía al inicio con la definición de mediador pero sí quiero dejar constancia de que esa demanda

sí gracias señor consejero podemos estas de acuerdo con el contenido de toda la moción que se aprobó

por un concreto punto cuatro que es el que

a su departamento y el que señala directamente al gobierno y es uno de los puntos que es evidente que no se ha cumplido a día de hoy es decir el gobierno no ha cumplido

que está reflejado en ese punto cuatro evidentemente ya se que no es un tema sencillo pero es un tema importante no es un tema sencillo pero es un tema importante y nuestra obligación es traerlo aquí tantas veces como sea necesario para tratar de resolverlo y puesto que se aprobó una moción

comprobar si el gobierno ha cumplido eso que este parlamento aprobó y no se ha cumplido no se ha cumplido y así lo dicen

que no se ha cumplido desde luego nosotros no pensamos que kontsumobide haya tenido una buena actuación nosotros pensamos que no ha atendido como se merecen los ciudadanos

los propios afectados han sido muy críticos con él y nosotros también nos parece que es una injusticia evidente cuando se produce una estafa lo lógico es reclamar todo el dinero que se le ha retrotraído

ese objetivo y sigue siendo ese nuestro

pues es claramente injusto muy limitado y lo han rechazado los propios afectados qué es lo que decía este punto cuatro de aquella moción el parlamento vasco insta al gobierno vasco al establecimiento de un servicio de atención a los afectados por las participaciones preferentes o subordinadas

donde se facilite la información y los medios necesarios no ha habido ni información suficiente ni se han dado

permanentemente los ciudadanos estafados ni información suficiente ni atención debida ni medios necesarios medios suficientes para poder ejercer cuantas actuaciones judiciales sean precisas en demanda de sus derechos esto era lo que se le pedía información y medios necesarios para poder ejercer cuantas actuaciones judiciales sean precisas en demanda de sus derechos y no solamente eso sino que se articulara un canal de ayudas para hacer frente a dichas judiciales se ha habilitado ese canal de ayuda señor consejero para facilitar que estas personas puedan reclamar judicialmente lo que les corresponde evidentemente

van a prestar ayudas a los estafados para que puedan presentar sus reclamaciones judiciales les van a atender como merecen les van a facilitar

sí o no era lo que se le pedía se aprobó

no lo ha hecho otros no han hecho otras cosas que también debían haber hecho evidentemente pero nosotros en este caso concreto y en relación a este punto nos dirigimos expresamente al gobierno aquí hay muchos responsables señor consejero responsable el parlamento vasco que modificó la ley de cooperativas

la comisión nacional del mercado de valores por no controlar este tipo de productos eroski y fagor como emisores del producto y quienes tienen el dinero

por los estafados las entidades comercializadoras el gobierno vasco y algunos partidos políticos que se han puesto de perfil y no han dado la importancia que merecen

de este fraude pero en todo caso nos dirigimos a usted y le preguntamos de nuevo sobre el cumplimiento de este punto cuatro de esta moción y sí van a cumplirla

estafa nosotros creemos en la separación de poderes ejecutivo

y judicial y nosotros no somos el judicial somos el ejecutivo la labor de kontsumobide debo decirle que creo que ha sido

impecable las personas que dan la información a cada una de las personas consumidoras que se acercan al instituto que son los funcionarios que trabajan en kontsumobide creo que han hecho todo lo posible por ayudar a esas personas y además creo que se han dejado muchísimo tiempo

desde el que del gobierno les tenemos en jornada

a una solución que ha podido no satisfacer a todo el mundo pero que era francamente compleja de buscar voy a aprovechar la ocasión para matizar

la propuesta como le estaba diciendo es el resultado del trabajo de mediación

durante los últimos meses lo cual no significa que tenga el aval del gobierno ni del departamento de salud ni de kontsumobide

ha sido hacer el trabajo de que lleguen a una propuesta y comunicar la misma la propuesta es el acuerdo máximo que kontsumobide ha sido capaz de alcanzar

voluntaria a la que han estado dispuestas a llegar ha señalado usted también que ha sido rechazada por las asociaciones de afectados de estos productos financieros tiene usted razón efectivamente hemos oído pronunciarse

en contra de la solución aportada nosotros también hubiéramos preferido que la solución hubiera tenido más cantidad económica no se nos escapa que setenta y cinco es más que setenta ochenta más que setenta y cinco y así

pero tampoco se nos escapa que la propuesta de solución es voluntaria e individual por lo que tampoco sería de extrañar

a la propuesta ofrecida como ustedes saben kontsumobide también ha estado en contacto con las asociaciones de personas consumidoras

de forma bastante continua sus sugerencias y reivindicaciones y los planteamientos también se han llevado oportunamente a la mesa de mediación con las partes

y otras no insisto kontsumobide

he venido hoy aquí a dar cuenta del cumplimiento de una instancia de este parlamento a pesar de que la solución no sea del agrado de las partes que esperaban que se les devolviera el cien por ciento de su dinero y hubiéramos estado francamente satisfechos de haber conseguido el cien por ciento del dinero que era el objetivo con el que hemos trabajado desde el principio tengo que comunicarle que el gobierno a través de kontsumobide realizó la labor a la que se le instó desde el parlamento

una propuesta nueva universal para todos

y los que no han reclamado a través de kontsumobide y sobre todo

gobernu honek kontsumobideren bitartez legebiltzarrak estutako lana egin du cada persona afectada tendrá en estos momentos la posibilidad de valorar

acudir a la vía judicial algo que nunca ha estado cerrado acogerse al canje propuesto por

y quedarse como está que es también una opción con el título que tiene cobrando los intereses en cualquiera de los tres casos lo más importante es que cada persona consumidora

ubera andrea como usted conoce yo no firmé el convenio

aunque estoy de acuerdo con él cuando me toque renovar el convenio

el informe al que hace referencia y que ha elaborado el departamento de salud analiza

la atención sanitaria pública lo voy a repetir atención sanitaria pública prestada a los ciudadanos de la comarca tolosaldea por los servicios concertados

concertadas en tolosaldea financiados por el departamento de salud con impuestos de los ciudadanos y financiados por el gobierno asistencia sanitaria pública no me avergüenzo de ello de ninguna manera ni del informe ni del convenio

que se priorizan los servicios privados concertados sobre los servicios sanitarios públicos porque esto no ocurre ni en la comarca tolosaldea ni en ninguna otra comarca de euskadi

el eje de nuestra planificación sanitaria no es la atención hospitalaria

la planificación sanitaria en este momento se centra en los ciudadanos con una definición muy clara potenciar de la atención primaria en un concepto de gestión integrada con la atención hospitalaria y coordinarnos lo más que seamos posibles con los servicios sociales por lo tanto respondiendo a su pregunta señora ubera pienso que el convenio suscrito con la empresa inviza

posible de los recursos disponibles en una comarca en la que efectivamente hay servicios que provee una empresa privada y vamos a decirnos la verdad

y con unas buenas comunicaciones posiblemente hoy en el actual contexto económico no tendríamos hospital comarcal hay muchas zonas en euskadi

más alejadas de sus hospitales de referencia que lo que está tolosaldea del hospital universitario por otro lado el concierto

ya le he dicho que no lo he iniciado yo lleva varias legislaturas

da un buen servicio este es nuestro empeño y lo vamos a conseguir vamos a seguir manteniendo un sistema sanitario público en tolosaldea

para que lidere y conduzca el proceso asistencial con respecto a la clínica un proceso asistencial integrado y en esta línea estamos trabajando y en esta línea vamos a avanzar para potenciar nuestro sistema sanitario público de calidad y universal no vemos ningún obstáculo

por la diferente titularidad de los recursos como no lo vemos tampoco por coordinar la atención sanitaria y los servicios sociales que tienen titularidades

y provistas también por centros privados eskerrik asko

mire no merece la pena hablar de generalidades me tiene usted aquí todas las semanas dígame usted concretamente qué servicios se han privatizado en sanidad

dígamelo que le voy a contestar una a una esan dizudan bezala

ez zaitez arduratu ubera andrea egon lasai hay quien está haciendo una cruzada por la titularidad del centro con una falta de respeto absoluto a los profesionales que prestan ahí un buen servicio desde hace muchos años el motivo desde luego no es la calidad del servicio prestado